eta haurrekoei el parlamento vasco condena los asesinatos así como toda manifestación de violencia contra las mujeres o de discriminación sexual entendemos que la violencia sexista es la expresión más grave

y qué pasa con el sector privado pues tenemos por ejemplo las recientes declaraciones del presidente de cebek muy crítico con las masivas convocatorias de ope porque según él desincentiva el espíritu emprendedor de los jóvenes

y se quejó de que haya calado la falsa idea según él

son precarias o malas e indicó textual que hay que gestionar con inteligencia el reconocimiento económico que merecen las nuevas contrataciones de los jóvenes bueno

hacer entre todos cómo pagar menos a estos jóvenes o puede ser cómo reconocer y valorar el conocimiento que tienen me gustaría que fuera lo segundo pero lo que sí sé es

porque los ejecutivos mejor pagados de las empresas del ibex treinta y cinco entre las que hay unas cuantas vascas

esto es noventa y siete coma siete veces más lo que cobraron de promedio los empleados de esa empresa y creo que empezamos a situar la cuestión aurreko astean ere akordio publiko pribatu

ematen las condiciones del programa lehen aukera para una persona con una titulación universitaria

mínimo es decir el que se recibe sin ninguna formación necesaria en muchos países es decir un graduado o graduada vasca en un empleo ajustado es decir trabajando en lo que se ha formado

un treinta y cuatro coma ocho por ciento menos que el empleo menos cualificado en inglaterra escocia o gales ese graduado también cobrara un treinta y ocho por ciento menos

menos respectivamente que el trabajador que menos cobra en bélgica países bajos e irlanda y comparando con luxemburgo un ochenta y cuatro coma dos por ciento menos

ni digo lo dramático es que a este gobierno

porque su consejera desde luego decía en la interpelación y cito también textualmente de la agenda de sesiones cuando usted me citaba los salarios que los jóvenes en otros países europeos

teniendo en cuenta los salarios medios que también esos países tienen respecto a lo que en euskadi tenemos sinceramente creo que son bastante proporcionales a lo que estos países europeos que ustedes ponen como ejemplo

además este sueldo mínimo también que el gobierno vasco da por bueno es un treinta y dos por ciento más bajo que la media de la contratación real

por qué ha establecido este valor el gobierno y aquí es dónde queríamos llegar porque los datos de todos los titulados que se han ido en busca de trabajo acorde a otros países es preocupante y responde al mismo análisis de la situación

en una economía socialmente responsable que denuncia la situación de titulados y tituladas y también se preocupa por lo económico los empresarios

pero la pregunta no es qué hacen ellos la pregunta ya que estamos en el parlamento es dónde nos situamos las fuerzas políticas

buscando un equilibrio entre las necesidades de la sociedad y las empresas

por qué el sueldo mínimo que está este gobierno para titulados universitarios formados es mucho más bajo que el salario mínimo de muchos países europeos por qué

cuáles son las prioridades como país porque desde luego si se estudia el ritmo de crecimiento de ingresos en los hogares entre generaciones que es un estándar habitual de comparación

los nacidos entre el ochenta y uno y el dos mil que han alcanzado los treinta no han experimentado ninguna mejora respecto a la generación décimo la del sesenta y seis a los ochenta

en la comunidad autónoma de euskadi no está produciéndose los datos indican de hecho que los millennials que han alcanzado los treinta tienen

y esta es la primera vez que ocurre no le preocupa a este gobierno y se debe desde luego en parte a que la respuesta del mercado laboral a la crisis ha afectado especialmente a los más jóvenes

de ofertas de empleo sino que las características de estas ofertas cuando se producen sueldos más bajos que el resto de los trabajadores jornadas a tiempo parcial eventualidad creciente

el incentivar las becas o los mileuristas desde luego contribuyeron a hacer estructural este problema y un momento que era el adecuado para el cambio para dar validez

a cómo se valoran los titulados universitarios no se produjo el proceso de ataque sistemático también y de descredito a los sindicatos por parte de portavoces institucionales

y cuando desde euskal herria bildu damos estos datos sabemos sabemos que el partido del gobierno nos comparará con los del vagón de cola nos dirá que vamos mejor que en otros sitios diciendo que además esto ha sido inevitable por la crisis bueno pues no es así no es así

y esto tiene una razón que se adoptaron medidas políticas para que fuera así porque está en manos nuestras tomar decisiones políticas para que esto sea así

bere jendea dela y en este país la parte correspondiente al trabajo de la renta nacional está disminuyendo

están empeorando los acuerdos en impuestos es para bajárselos a los empresarios no desde luego a las personas y las reformas laborales favorecen la precariedad

muchos jóvenes se van por razones laborales además a otros países o a otras comunidades tenemos una situación paradójica porque tenemos

más adecuados tenemos desde luego una relación de riqueza suficiente para la sociedad tenemos el nivel más alta por regiones de europa de formación en los tramos treinta treinta y cuatro tenemos un cincuenta y cuatro coma dos el más alto en todas las regiones de europa tenemos sin embargo una industria con un nivel tecnológico que no es tan elevado

la recuperación económica con ofertas de empleo precario además una brecha salarial entre sectores muy importantes se elevaba a finales de dos mil diecisiete

y a muchos desde luego la situación de estos jóvenes titulados cobrando menos de mil euros nos parece escandalosa hay economías como la nórdica que nos demuestran que esto es evitable este gobierno tiene un planteamiento para esta generación que vaya más allá de la precariedad

y podemos alcanzar un gran consenso social y político que nos permita avanzar en la senda de una economía del conocimiento

en lo ambiental y en lo social podemos no dejar a una generación atrás y esa es la propuesta que hoy euskal herria bildu le trae aquí una invitación para pasar de políticas

irudikeri bat es una realidad cotidiana del día a día de nuestra juventud no es una elección en la mayoría de los casos sino una obligación

muchas veces los domingos en algún periódico en muchos programas de televisión vemos casos de éxito de gente joven por el mundo con proyectos de vida desarrollados pero esa

no hay una vida digna con salarios de miseria ni aquí ni en madrid ni en berlín si durante un tiempo los estudios garantizaron cierta

es una cosa que ha existido siempre y que es parte de este sistema en estos momentos el paro juvenil en euskadi ronda el treinta por ciento

de vida de nuestra juventud porque además las políticas las políticas que en esa transacción de los partidos del gobierno las políticas continuar con esas políticas no deja de ser poner

y para colmo si la situación de paro juvenil no es sangrante tenemos el acuerdo que firmó la semana pasada el gobierno con confebask y esas declaraciones de esa encuesta que confebask hizo entre sus

en las que decían que el sesenta por ciento de las razones por las que no encontraban trabajadores y trabajadoras era por condiciones de formación pero que el cuarenta por ciento era por actitud disposición e interés de los trabajadores y las trabajadoras a mí me parece esto una broma con las condiciones que están ofreciendo en este momento en nuestro país y que el gobierno ese tipo de situaciones me parece por lo menos de vergüenza porque nos piden les piden una carrera y les piden un máster y luego otros más y además procesos de doctorado y no con condiciones

del país vasco en nuestra universidad a doctorandos cobrando novecientos euros netos esa es la situación de euskadi y de la que no estamos

porque a mí me preocupa la huida de jóvenes formados y formadas pero me preocupa cualquier huida de euskadi de cualquier persona independientemente de su formación y eso es una sangría que no estamos sabiendo parar porque euskadi no está ofreciendo alternativas de vida digna

a estas personas y cuando ofrecemos alternativas ofrecemos un programita para que vuelva el talento

qué hace el resto el resto qué está condenado a la precariedad permanente aquí o fuera yo creo que eso no es tolerable porque siempre igual que las decisiones que se tienen que tomar aquí

voluntaria y digo fuera o aquí cada cual tiene que tener derecho a desarrollar su proyecto de vida

sola un proyecto de vida compartida o un proyecto de vida con hijos un proyecto de vida sin hijas

y yo creo que en este parlamento creo que todos queremos tener que esta sociedad tenga una vida digna no puede permitir que la gente no pueda desarrollar sus proyectos de vida en nuestro y ahora mismo ese proyecto de vida vuelvo a decir no cabe con estas actuales políticas con estos parches del gobierno porque la emancipación en euskadi los datos están ahí tenemos la media de europa con veintiséis años en euskadi más de treinta

de nuestro país qué sueldos les animaría a preguntar qué sueldos están cobrando

euros qué están cobrando el resto de nuestros y nuestras jóvenes qué horarios tenemos qué horarios tienen son horarios compatibles con la vida

por ejemplo en el área urbana de bilbao qué coste tienen las matriculas con la universidad

en la universidad del país vasco al margen de los oficiales que son quizás

y lágrimas de las familias de la clase trabajadora de euskadi se tienen que pagar en las universidades públicas y privadas

aukera eso es lo que creo que tenemos que pensar que con esos datos con estos sueldos con estos números es imposible desarrollar un proyecto de vida propio en euskal herria

euskal herria bildu en este punto que se suma a otras que se han desarrollado en las políticas de juventud y en otro tipo de iniciativas y por eso también hicimos la enmienda de transacción que finalmente vamos a o que hemos presentado con

de los novecientos euros netos de los doctorandos

organizaciones integrantes del mismo avalan esto que estamos diciendo evidentemente igual que denunciado las frases la frase de confebask que ese informe que se menciona en la iniciativa de bildu

esa preocupación que tenemos que mostrar ante esos mensajes que se

a los jóvenes cuestionando el valor la preparación la productividad ese mensaje de ese informe que curiosamente el cuarenta por ciento al menos de los empresarios afiliados a confebask

parece que avalan y lehen aukera es verdad que lehen aukera ha evolucionado por suerte desde el programa inicial pero creo que quedan muchas demandas por atender creo que quedan muchas demandas

de euskadi firmadas entre otros por nuestras organizaciones juveniles de euskal herria bildu

por juventudes socialistas recomendaciones que señalan que

un salario acorde a los convenios y un salario acorde a las horas trabajadas que tiene que tener cláusulas

de las empresas de destino que no lo tiene que tiene que tener elementos para

prologar la estancia y también un seguimiento por parte del

y por último proponíamos respecto al papel del gobierno vasco y de la

que se asegure que el personal docente que el personal de administración y servicios y todo el personal de la administración pública los organismos

o de las empresas subcontratadas por la administración tengan unas condiciones laborales dignas que creo que tampoco es mucho pedir pero por desgracia creo que el debate de hoy se va a quedar

no vamos a recibir más que el apoyo en este caso de elkarrekin podemos y de euskal herria bildu a esta enmienda de transacción

la verdad que la enmienda de transacción que propone el gobierno no deja de ser en una línea el gobierno continuará única y exclusivamente tiene tres puntos pero únicamente dice

hoy por lo menos para eso y por lo menos que esta iniciativa sirva una vez más para anunciar en tribuna

por aprender por enseñar por poner copas por reponer en los supermercados o por cuidar

una vida digna y esa vida digna aquí y ahora y con estas políticas no cabe eskerrik asko

a nuestro grupo le ha parecido muy pertinente la presentación de esta moción porque desde luego creemos que es un problema reconocido por todos reconocido por todos pero hagamos un poco historia

no es un problema de hoy en el año dos mil seis y dos mil siete en los años anteriores

euskadi tenía ya el número de entonces eran licenciados más alto de toda españa y teníamos

autónoma vasca y ese fue un problema que el grupo popular lo llevó denunciando años y años el hecho de que nuestra juventud se iba hacíamos pequeños sondeos entre conocidos etcétera etcétera y siempre veíamos que en todas las familias

otro a madrid este es un problema estructural

no es un problema de ahora se nos habla también

a ver seamos sinceros la crisis se ha tenido que resolver de la forma más dolorosa que se puede resolver que es aumentando la productividad y cuando uno no tiene control sobre su moneda cómo se aumenta la productividad se aumenta la productividad con mayor trabajo por menos salario cosa horrible

cosa que ninguno querríamos decir se nos habla de países nórdicos a ver los países nórdicos no llegaron a los niveles de crisis a los que llegó

de declararnos en quiebra y este ha sido un proceso traumático doloroso y en el que creo que todos estamos empeñados

nos decía la rectora como ya se ha mencionado aquí que hay que cuidar el talento claro que sí estamos totalmente de acuerdo y que los salarios universitarios de universitarios

cierto y el dieciséis por ciento era

y esa ha sido la salida de nuestra crisis aumentar la productividad y eso es trabajar más por menos dinero de las cosas más terribles que le pueden pasar a una sociedad sobre todo por una razón porque lo que mueve una sociedad

el pensar mañana estaré mejor que hoy

tiempo dos tres años lo que se solía llamar

había casi una convicción generalizada de que mañana

esa es la situación nuestro grupo primero como veníamos diciendo ha denunciado este éxodo

de jóvenes con alta formación a otras partes de españa y a otras partes de europa y también del mundo durante mucho tiempo antes de la crisis

la crisis ha supuesto el aumento de la productividad

dolorosísimo pero vamos a ver bueno y nuestro grupo también ha prestado su apoyo para luchar contra esta situación

solamente en el presupuesto de este año en el programa de retorno juvenil que estaba cifrado en un un millón quinientos mil euros nosotros pusimos una enmienda que se aprobó

el problema es que mejor no preguntamos cuántos han retornado porque creo que se pueden contar

desde luego dedos de las dos manos me sobran de una sola no pero lo hemos intentado y para empleo juvenil en fomento del emprendimiento que había quinientos mil euros

nadie podrá reprochar al grupo popular que no ha apoyado y que no ha puesto el hombro y que no ha trabajado para superar

hay una cosa que nos tiene que hacer reflexionar esta moción se basa en datos de dos mil dieciséis miren

que los datos de dos mil dieciséis están obsoletos

el cambio que ha podido suceder de dos mil dieciséis a dos mil diecisiete

significativo vivimos en un momento de cambios tan acelerados que si a mí ustedes me plantean unos datos de dos mil dieciséis

que los actuales van a ser distintos y veníamos preparando esta intervención

tenía los datos por ejemplo de la epa del último trimestre y decía no los datos son distintos las cosas van mejorando se está creando empleo ese empleo

he oído los datos de la epa del primer trimestre de dos mil dieciocho y no son datos satisfactorios

la fragilidad de las situaciones ahora hacen que datos de dos mil dieciséis sean obsoletos

del último trimestre de dos mil diecisiete se han quedado obsoletos

de dos mil dieciocho hay un dato muy preocupante ha crecido el empleo sobre todo en el sector privado

se ha reducido el desempleo en el sector público pero ha crecido en el sector privado dato muy muy preocupante estas cosas las estoy exponiendo aquí nuestro grupo las exponen para que vean ustedes que la fragilidad de la situaciones y lo cambiante y lo rápidamente que cambian

tomar medidas fijas decididas que sirven para hoy pero que en seis meses pueden no servir y por tanto nosotros nos queremos volcar en el empleo juvenil que viene de periodos

pero que no es el universitario a ver nosotros estamos teniendo en estos momentos un éxito altísimo en la formación profesional y sobre todo en su aspecto dual y eso es algo que nos tiene que hacer

no solamente tenemos unos índices de empleo altísimos no solamente hay veces que no se cubre la oferta de trabajo s e necesita más gente

esos puestos de trabajo no se llenan porque no hay personal suficiente para llenarlos si no que los salarios los salarios están siendo muchas veces

a los que consiguen los titulados universitarios es decir si vamos a enfrentarnos al problema del empleo juvenil y a la relación que tiene

o tratar solamente el problema de los titulados universitarios que es importante sin duda y en el que tendremos que trabajar

van en este sentido si no tendremos que tener una panorámica más general y saber que el empleo juvenil

en procesos relacionados con la formación profesional está yendo bien y está yendo bien también en términos económicos

una de las asociaciones que son varias las empresas ya

los alumnos que salen de fp tienen sueldos superiores

empresas entonces nuestra postura sobre todo es no fijarnos en los datos frágiles y contingentes que cambian de día a día y abrir todo

a todo el empleo juvenil proveniente de procesos de formación que es mucho más que los que vienen de procesos universitarios
gracias eskerrik asko bengoechea andrea

yo no sé para lo que se levantan otros parlamentarios yo sí me levanto para intentar mejorar siempre las condiciones de aquellos ciudadanos a los que representamos en esta cámara

si no se toma usted ni la molestia de saber cuál es la opinión o la posibilidad de entente que hay entre las distintas formaciones políticas y solamente acude a la formación hermana en la que le resulta sencillo

con el acceso al empleo de los universitarios y pegamos la situación de los postdoctorales y los predoctorales y tal

es fácil luego no se tire las manos a la cabeza si el resto de formaciones políticas pues no lo apoyamos comenzamos el debate

que la titula como relativa a los salarios que deberían recibir los y las jóvenes que tienen un título oficial de licenciatura grado y máster universitario y la moción tiene su origen en la interpelación que sustanciaron el pasado pleno de control

hemos tenido una profusión de datos importante yo desde luego a entrar en ellos porque oportunidad hemos tenido de leer el diario de sesiones y de escuchar también las intervenciones previas a la nuestra pero que de esos diferentes estudios también hay otras conclusiones porque hay indicios positivos de mejora en el mercado laboral juvenil

que es también unas características dentro del desempleo juvenil sigue constituyendo una de las más importantes preocupaciones no solamente en euskadi no solamente en españa sino también a nivel europeo

otras conclusiones y yo le voy a destacar dos una dice que los dos factores

de desempleo entre los jóvenes son la falta de cualificación la cualificación inadecuada y la falta de experiencia laboral esos son dos de los problemas troncales para las causas del desempleo juvenil y otra de las conclusiones que también se extrae de esos estudios es que los

duración pueden ser permanentes durante el transcurso de toda la vida de la persona en cuanto a las perspectivas de los ingresos que pueda llegar a obtener por lo tanto creemos que es a través de la completa y adecuada cualificación y de la experiencia laboral del ofrecimiento de la experiencia laboral donde se generan realmente

de nuestros y nuestras jóvenes por ello se constituye para nosotros como una prioridad dentro de los planes de actuación que tiene que orientar el gobierno vasco

de nuestra juventud y habrá que actuar en varias direcciones ahí tienen ustedes el plan marco de empleo reactivación económica y el cuarto gazte plana que tiene un elenco

ámbitos y de diferentes departamentos pero yo me voy a ceñir en concreto en dos que son los que creo que hoy se traen a colación aun a pesar de que luego en el punto tres hablaremos

que ha venido instaurado con la crisis y con las reformas legislativas que se han realizado del mercado de trabajo

una de las direcciones en las que hay que trabajar tiene que ver con las dificultades como les digo

cuando se finaliza la fase educativa y se tiene que dar el salto al mundo laboral cuando pasas de ese mundo que tú controlas y que sabes exactamente cuánto cuál es tu obligación diaria y cómo después

en el mercado laboral cómo entras ahí y los datos lo que corroboran

resulta muy complicada debido fundamentalmente a la falta de experiencia o a la necesidad de un mayor desarrollo de competencias que es lo que exigen o demandan las empresas que son las que ofertan los puestos de trabajo

o se deben de encuadrar los programas para un mayor acercamiento y velocidad en el tránsito que se debe realizar del ámbito educativo al ámbito laboral y es cierto no es

tenemos la formación profesional y tenemos datos diferentes entre lo que está siendo la inserción en el ámbito universitario y en el ámbito de la formación profesional pero se olvida esta iniciativa de hablar también de esa cuestión la otra dirección en la que creo que tienen

los recorridos de los programas es facilitar la primera experiencia

con aquella formación que han recibido es decir que les den la posibilidad de mejorar su empleabilidad porque su conocimiento teórico lo tienen es un alto conocimiento teórico pero le falta ese conocimiento práctico que es necesario para completar

donde se enmarca el programa lehen aukera

es apoyar no nos olvidemos la contratación de jóvenes licenciados titulados con formación profesional o solamente con certificado de profesionalidad

que estén en situación de desempleo es decir es para aquella gente que no tiene experiencia laboral que no ha conseguido acceder al mercado de trabajo tiene que ser en empleos que obligatoriamente estén relacionados con su cualificación no en cualquier tipo de empleo es decir contratos para jóvenes con licenciatura con diplomatura con ciclos formativos con certificados de profesionalidad sin empleo

el programa lehen aukera y esta convocatoria de ayudas es cierto establece condiciones mínimas mínimas que no máximas eso hay que dejarlo también claro en unos salarios que a jornada completa van desde los once mil doscientos euros anuales hasta los dieciocho mil y si eso no estoy equivocada significa

la persona que es contratada y si yo no soy mala en matemáticas eso significa que el salario mínimo mensual de un licenciado

euros al mes porque está retribuido en catorce mensualidad con lo cual cuando usted me dé el salario bruto mensual me lo tendrá que dar en las doce mensualidades o especificarme que un trabajador cobra doble en julio

euros anuales es un programa que si usted lo analiza en cuanto a las cuantías económicas que destina lo que incentiva fundamentalmente es la contratación indefinida porque tiene contrato en prácticas y contrato indefinido

si el contrato que se formaliza es un contrato indefinido y dentro de la contratación temporal en prácticas que subvenciona también lo hace a la menor duración de esta tipología de contrato porque la subvención que se reciben en los seis primeros meses es casi idéntica a la que se recibe si es por un año por tanto

mayor incentivación a la contratación indefinida segundo mayor contratación si es en prácticas de menor duración que si es de máxima duración por la tipología del contrato deben ser modificadas sus cuantías esa es

porque solo mencionan ustedes a los licenciados es una posibilidad yo no se la niego puede ser una necesidad y que puede resultar seguramente

consideramos necesario que debe realizarse por parte del gobierno vasco de este programa y de todos los programas que tienen que ver con la incentivación de la entrada en el mercado laboral

autónoma por eso lo que nosotros le proponíamos en nuestra enmienda y que no han tenido interés por saber cuál era el contenido es que en el desarrollo de los programas específicos que tenemos para el fomento del empleo juvenil y que están recogidos en programas que tienen que ver

no estamos hablando de datos anteriores dos mil diecisiete dos mil veinte con proyección a futuro entre ellos también el que usted menciona lehen aukera

poder incorporar las mejoras que pudieran ser necesarias pero suele ser así se implanta un programa se le da tiempo de vida

en función del resultado si hay que incorporar mejoras o no se realizan y lógicamente queremos que de todo esto se dé cuenta lógicamente a la comisión de empleo políticas sociales y juventud para finalizar mi intervención y a modo de conclusión nosotros y ustedes y yo creo que todo el parlamento conoce cuáles son los factores que afectan al empleo de las y los jóvenes eso creo que no lo cuestionamos planes y programas el gobierno vasco los tiene puesto en marcha porque esto les preocupa

para remover los obstáculos para el acceso al mercado laboral de los jóvenes y para promover su autonomía están en marcha periodo dos mil diecisiete dos mil veinte

creemos que se deben conocer sus resultados y si de este conocimiento se detecta las necesidades implantarlas pero ese es el procedimiento ese es el camino por ello no podemos apoyar la moción que usted hoy nos propone

probablemente uno de los colectivos que más ha sufrido las consecuencias de la reciente crisis económica por suerte ahora la economía atraviesa una tendencia positiva y nos encontramos en condiciones de mejorar las condiciones laborales de las personas en general y también del colectivo de personas jóvenes o de la juventud

mejorando los salarios y creo que en eso todas y todos estamos de acuerdo no tanto quizás en el diagnóstico que se hace en la moción original y es que repasando algunos datos vemos también que cuatro de cada diez personas jóvenes menores de veinticinco años

etapa formativa o también que la tendencia de reducción de las tasas de desempleo es positiva en euskadi ya que desde dos mil catorce hasta dos mil diecisiete

en datos de finales de dos mil diecisiete también tenemos otros estudios que hablan de las expectativas que tienen las personas jóvenes como puede ser el aurrera begira allí

y vemos por un lado que aquellos que están empleados la concepción o la percepción que tiene del riesgo de pérdida o precarización de su trabajo

en situación de desempleo también ha mejorado que estos datos podrían ser mejores creo que también todas y todos estamos de acuerdo pero en ello y hay que reconocerlo está trabajando el gobierno cada día con compromiso y con responsabilidad compromiso y responsabilidad que se traslada

una juventud además que en muchas ocasiones debe iniciarse en el empleo conseguir esa primera experiencia laboral que es tan importante y ahí es donde programas como lehen aukera adquieren una importancia vital no consiste simplemente en una primera experiencia laboral sino que además permite tener un salario digno

y sobre todo y más importante permite conseguir experiencia que es su objetivo e iniciar un proyecto de vida entre los que somos jóvenes

un buen ejemplo del tipo de programas e iniciativas que se pretenden

no se trata de un programa de becas y eso debemos tenerlo claro sino de un recurso cuyo objetivo es mejorar la empleabilidad de las personas jóvenes

además debe ofrecerles esa primera oportunidad laboral mediante la contratación efectiva de ellos y para que puedan acceder al propio mundo laboral que en ocasiones resulta algo tan difícil

orduei dagokienez como vemos se trata por tanto de un programa completo

que es tan importante para que los jóvenes accedamos al mercado laboral e iniciemos nuestra carrera profesional

consiga dar pasos también lo haga en consecuencia los salarios que percibimos

en lo que respecta al plan estratégico de empleo dos mil diecisiete dos mil veinte es importante destacar que dentro de su tercer ámbito y es el que trasladamos además en la enmienda a la totalidad suscrita con el grupo socialista el que es relativo al fomento del empleo juvenil se prevé entre otras diferentes

y un total de nueve cada una de ellas además con sus propios objetivos e indicadores en estas se recogen una serie de líneas que creo abarcan todo el entramado que puede concernir

pasan desde la transición educativo laboral a través de programas específicos análisis y seguimiento acompañamiento el propio programa lehen aukera como tal el emprendimiento juvenil extendiendo los valores del emprendizaje al ámbito educativo tanto de formación profesional como de la universidad los planes locales y comarcales de empleo los programas de relevo y renovación tanto en la empresa privada como en el sector público vasco el apoyo al retorno juvenil el talento joven

bigarren hori laugarren gazte plana izango litzateke vemos por tanto que el compromiso de este gobierno con la empleabilidad es trasversal y lo trasladamos en la enmienda a la totalidad suscrita con el grupo socialista una enmienda que

y el eje uno del plan joven que quiere que se desarrollen y que pretende que sean que la comisión de políticas sociales sea informada de las mismas besterik gabe eskerrik asko

acaba usted de decir que ven el compromiso de este gobierno sí

eso es lo que hemos traído aquí con qué se está comprometiendo este gobierno señora

estamos de acuerdo con el diagnóstico todos es imposible no estar de acuerdo en el diagnóstico

aparece en la parte expositiva precisamente recogemos que hemos registrado antes del petitum con lo cual creo que efectivamente el diagnóstico

cualquier tipo de datos de referencia solo podemos llegar a uno la situación

de empleo o de desempleo de los jóvenes es muy mala han sido los especialmente afectados por la crisis efectivamente esto es así por eso la pregunta es qué vamos a hacer

porque usted señora castelo decía hay datos positivos de empleo juvenil qué son datos positivos porque no vamos a negar y creo que también

que se está produciendo una mejora en los niveles de contratación

pero qué son datos positivos qué hay detrás de esos datos cuáles son los datos de sueldos de

o de tipos de contrato cuáles son los datos cuando leemos por ejemplo

qué quiere decir datos positivos lo consideran positivo ustedes precisamente lo que también nos dicen los datos que es que la generación de los millennial cuando llega a los treinta está cobrando sustancialmente menos que la generación

es decir qué son datos positivos y sobre todo están hablando de lo que está planteando el mercado y esa es la cuestión vamos a dejar que el mercado simplemente actúe o se va a hacer política porque usted todavía pertenece al partido socialista y que yo sepa el partido socialista al menos sería de los que se serían favorables a intervenir entonces

rija no tengo ningún problema son liberales la cuestión es desde la izquierda

pero usted quiere plantear que realmente el gobierno no tiene que intervenir al revés si yo le estoy planteando también tanto a usted como al pnv que intervengan confío en que también puedan creer en eso

pero cuál es la respuesta que nos están dando primero que hay que dejar funcionar al programa el programa ya lleva tiempo funcionando y le digo

oficial que aparece sobre lehen aukera se recoge perfectamente remuneración bruta anual mínima incluidas pagas extras

es tal cual y qué es lo que se da este dato mínimo cuál es el mínimo que evidentemente es el mínimo es que tal y como defendía la señora bengoechea también que hablaba de fp

estamos haciendo una referencia a los sueldos de los titulados universitarios porque esto viene a raíz de una interpelación a raíz de unos comentarios desde la universidad pero evidentemente somos los primeros interesados en que los que la fp tengan las mismas condiciones de hecho también en la enmienda transaccional cuando décimos que se revise el programa lehen aukera señora castelo no décimos que se haga para los universitarios puede usted leer la enmienda que desde luego me he preocupado en llevársela a ustedes antes de que empezara la sesión para que la pudieran ver que se le ha acercado desde luego dice claramente que lo que pedimos es que

porque es lo que plantean porque es que ustedes están diciendo que para los ciclos formativos de grado medio una remuneración bruta mínima de ochocientos euros ochocientos euros

o sea eso es lo que pedimos que el mínimo el mínimo es que incluso se acerque más a las condiciones medias del mercado

que lo que este gobierno y esto sí es política establece como condiciones mínimas

el mínimo que ustedes estén planteando precisamente se acerque a la media real del mercado

estamos a favor de hacer políticas para los jóvenes para tirar el mercado para arriba nos preocupa la generación nos preocupa la falta de ingresos y queremos tirar para arriba o no nos preocupa

tomémoslas si precisamente aquí tienen ustedes la posibilidad de llegar a un acuerdo muy amplio entre muchas fuerzas

y vamos a actuar para tirar para arriba los salarios de la gente joven y la otra opción por supuesto es dejar hacer

de la moneda y porqué no podemos hacer supuestamente otras políticas que se pueden hacer pero el diseño de esa arquitectura que nos impide hacer todo ese tipo de políticas lo han hecho ustedes partido socialista y partido nacionalista vasco en europa no

miren un poco en su casa porqué no tenemos esas herramientas y

álvarez el fomento del emprendimiento

para un porcentaje para determinados puestos de trabajo no puede ser lo estructural para las políticas juveniles porque además qué es ser emprendedor los autónomos de deliverro de glovo son emprendedores y emprendedoras os hago esa pregunta a ver si opinan lo mismo

de nuestro país con unas condiciones de esclavitud totales

y lo mismo le digo a la señora bengoechea está muy bien todas las propuestas que hacen pero el gobierno de españa es responsable

del estado que se fueron a buscarse la vida fuera miles también de vascos y de vascas yo creo que tenemos que ver la globalidad

todo lo que tenemos encima de la mesa y señora castelo pues sí evidentemente no me he levantado para blanquear este plan para blanquear esta enmienda y por eso hemos hecho

llamado la iniciativa es de euskal herria bildu nosotros trabajamos ayer con ellos seguro que

esa apelación a que si están de acuerdo con los puntos de la enmienda que los dos grupos de la izquierda de esta cámara si se quieren sumar esos dos grupos de la izquierda todavía tiene tiempo pero yo le preguntaría a sus votantes si no están de acuerdo con que el parlamento vasco muestre la preocupación por los datos de precariedad juvenil

de la política de retorno que no está consensuada con todos los agentes juveniles o que si no está de acuerdo con que los trabajadores jóvenes no tienen

dicen y avala su gobierno con ese acuerdo con confebask o mejorar las condiciones del lehen aukera con mejorar las condiciones de esos novecientos euros netos que cobran las doctorando de nuestro país o con tener sueldos dignos en la administración única y exclusivamente una declaración

bildu única y exclusivamente lo que nos piden ustedes es que firmemos el punto uno el punto dos el punto tres que es el gobierno va a continuar haciendo lo que sigue haciendo

de la mesa y que sigamos haciendo lo mismo o sea que sigamos avalando sueldos en muchos casos precarios y que evidentemente

que pague más de lo que está establecido en el mínimo de lehen aukera pero estamos blanqueando el mínimo estamos blanqueando ese mínimo de precariedad

partidos del gobierno y

mejora pero lo que no mejora es el reparto de la riqueza que generamos y que generan los y las

en este país porque los datos están encima de la mesa son miles y miles y miles y miles de contratos los que se hacen cuántos puestos de trabajos se crean realmente y efectivamente en este país qué condiciones de empleo tienen esos salarios yo seguramente usted su cuadrilla

qué salarios qué condiciones qué expectativas vitales tienen qué hipotecas tienen qué

porque como decía comisiones obreras lehen aukera en muchos casos no es una primera experiencia laboral sino que es una primera experiencia de precariedad con dinero

y es una primera experiencia que no permite una vida digna en muchos casos y son casos con nombres y apellidos de ciudadanos y ciudadanas de jóvenes vascos y vascas porque vuelvo a decir lo ha mencionado también usted o sea el ser entrepreneur como está de moda

del gobierno no va a solucionar la política estructural de juventud ni la vida de la mayoría de los jóvenes necesitamos sueldos dignos salarios dignos

garantizar unas condiciones estables exigir a las empresas que reciben subvenciones que las utilicen y que cumplan con lo que tienen que cumplir y que además sean puestos de trabajo que se estabilicen en el tiempo porque

qué pues después esa misma empresa como viene lehen aukera que

se puntúa en la continuidad por ejemplo de una beca anterior en esa empresa ha entrado el programa lehen aukera es decir empresas que reciben durante

pagar menos también a sus trabajadores y esto es algo que también están criticando los sindicatos que

de los programas tanto de becas como de lehen aukera eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna

bueno quiero anunciar en primer lugar que vamos a retirar nuestra enmienda y vamos a votar a favor de la enmienda de los grupos que apoyan al gobierno pero quiero decirlo

no la podríamos suscribir porque nos cuesta bastante hacerlo y nos cuesta bastante hacerlo por qué porque nosotros fundamentalmente lo que encontramos en todos los problemas que estamos analizando y sobre los que estamos debatiendo aquí

falta de autocrítica por eso nosotros dábamos la bienvenida

la moción y le dábamos la bienvenida porque es que esto es un problema real es un problema real

trabajar más ganando menos algo tan duro en el momento en que la economía

es el momento en que se revierta ese proceso

y no vemos que el gobierno verdaderamente esté apoyando la reversión de ese proceso entonces vamos a votar a favor pero ya les digo

porque nos parece que adolece de una falta de autocrítica muy grande luego por otro lado

una mentira repetida cien veces se convertía en verdad pues

es un tranquillo que se usa en política y eso se lo digo

que siempre habla de la precariedad de la precariedad de la precariedad mire saben ustedes que en estos momentos hay menos empleo precario que entre los años dos mil seis y dos mil ocho

en estos momentos el empleo precario es del veintiséis por ciento triste muy lejos muy lejos de las cifras de precariedad en el resto de europa con una salvedad que unas empresas

muy alto supone una gran estacionalidad y hay veces que confundimos estacionalidad con precariedad pero incluso tomando estacionalidad

del laboral es del veintiséis coma dos por ciento y es inferior a la que había entre los años

es que es la gota malaya no hay intervención que no diga que la precariedad y la precariedad y por la reforma laboral etcétera

hemos conseguido tener una precariedad menor que en los años dos mil dos dos mil ocho vamos a ver volviendo y luego ya

detectamos todos los problemas pero qué alternativas plantean ustedes en sus modelos sociales en sus modelos

este tipo de situaciones es que lo único que han conseguido es empobrecer terriblemente a las comunidades donde ustedes están gobernando

usted dice que en europa que los que hacemos este tipo de políticas en europa somos partidos como

y saben qué europa es probablemente el continente del mundo donde se alcanzan grados de bienestar mayor con todos los defectos con todos los problemas que tengamos de todas maneras para terminara rápido rápido ya yo lo que les pediría

primero que el plan joven del que ustedes hablan el cuarto debiera tener una adenda para incorporar todas las

se indicaba que había que corregir cosas y el cuarto plan joven no ha corregido nada y eso les pediría a ustedes que hicieran una adenda

pero sin incluir las consecuencias y lo que había que mejorar

y luego respecto del otro plan nos interesa mucho que fomenten ustedes

un modelo que está resultando vamos a intentar ponerlo en marcha y a ver si conseguimos

a los que hemos conseguido con la fp por lo demás retiramos nuestra enmienda y votamos aunque no la podemos suscribir la de los grupos que apoyan al gobierno

la precariedad la temporalidad la parcialidad la retribución la media de retribución no afecta solo a la juventud esta es una de las consecuencias que ha tenido

a la que nos ha conducido el partido popular reforma tras reforma viernes viernes se podrá repetir muchas veces que ahora hay menos precariedad pero solamente lo dicen unos y eso a veces habría que hacérselo mirar por coherencia no se puede decir que ahora hay menos empleo precario y que lo que ha habido es una devaluación dolorosa de los salarios

y tener un mejor competitividad sin necesidad de que todo lo hubieran pagado quienes lo han pagado por tanto la especialidad que tiene el desempleo juvenil

no tiene que ver bajo nuestro punto de vista con respecto a la situación en la que luego se mantiene

y también al partido socialista le preocupa le ocupa y además llega a acuerdos en este caso en concreto cuando hablamos del desempleo juvenil y cuando ustedes hacían esta

que esa juventud que se forma tenga ese primer acceso al mercado de trabajo no es el problema de los primeros seis meses no es el problema de los primeros seis meses esos primeros seis meses ese primer año es para que ellos tengan esa formación práctica que no consiguen en la universidad por eso sí que es cierto lo que dice la señora bengoechea y es que hay que explotar ese sistema de universidad dual de formación dual formación profesional dual que sí está funcionando porque los datos son muy diferentes

lo dicen las declaraciones de la rectora de la upv que les han servido a ustedes de base en su justificación

se ha colocado ya en un ochenta y tres coma veinte por ciento y todos los indicadores apuntan a que va a seguir creciendo y decía ella ustedes no la han escuchado pero ella lo decía la rectora decía confío en que los datos concretos en euskadi que no los conocía porque de los que estamos hablando es de la situación general de españa del informe de la crue

que se publicarán en los próximos meses porque es cierto y lo decía también el señor

no tenemos los informes ni de los resultados de los programas ni de los resultados de la situación de los universitarios porque no se han publicado todavía y aun así no queremos esperar a tener

sean mejores que los que refleja el estudio de la crue y también decía una cosa y es que apenas de uno de cada cuatro que es donde ella marcaba la franja se colocaban en el tramo mil doscientos mil quinientos que era el que ella marcaba como adecuado igual para la entrada porque

entonces yo le voy a recordar y usted puede hacer lo que quiera dieciocho mil euros significa un salario bruto mensual de mil quinientos quince mil doscientos euros

tiene que empezarse igual por abajo pero ojala ningún trabajador cobraría nunca por debajo de las tablas que marca este programa igual esa fuera siempre el punto de partida de todos no solamente de los jóvenes sino de todos los trabajadores al inicio

están más protegidos de la precariedad porque las condiciones laborales de la administración pública han sido mucho más cuidadas y decía que

son los graduados que tienen que ir al sector privado porque en la administración pública no existe este problema los salarios están fijados y donde se puede actuar es en convocar más o menos ope y en eso también está este gobierno en el que participa el partido socialista y nosotros tenemos claro que además de mostrar la preocupación que al señor

a nosotros no a los socialistas nos suele gustar implicarnos en la influencia dentro de las políticas públicas porque cuando se influye en las políticas es cuando se pueden dar soluciones posibilidades

pero con los que nunca es capaz de llegar a un acuerdo que signifique que usted se tenga que mojar eskerrik asko castelo andrea

zurea da hitza eskerrik asko legebiltzar burua señora larrion el compromiso de este gobierno
con la empleabilidad de las personas jóvenes creo que es transversal y además cuenta con planes programas iniciativas

incluso se prevé una inversión de más de cien millónes de euros para intentar ponerlos en marcha

jóvenes tengan una oportunidad laboral para que puedan acceder a un mundo cada vez más complejo y competitivo como es el mundo laboral que requiere de formación que en muchas ocasiones ya la tienen pero también de experiencia y es a través de las diferentes iniciativas con las cuales se quiere conseguir no creo que estemos favoreciendo la precarización del empleo en base a la remuneración bruta que viene recogida en la convocatoria de lehen aukera

pretende que la persona joven que los jóvenes iniciemos y desarrollemos nuestras carreras profesionales y a partir de ahí

para ello como digo se están desarrollando programas iniciativas etcétera y el reto es claro que es abordar por un lado la precariedad y por el otro mejorar también los salarios y las remuneraciones

programa de reactivación económica y empleo del gobierno vasco en el año dos mil diecisiete vio que se promovió el empleo

y luego también hay que destacar que está claro que únicamente no solo las instituciones tenemos responsabilidad en este asunto sino que también

de instituciones por supuesto y también de agentes sociales para ponerlas en marcha hala ere ez gara honekin guztiarekin konformatzen eta

nire koadrilaren inguruko eztabaida hori no sé hasta qué punto

su moción hacían referencia a la preocupación que muestra el parlamento si eso también hasta qué punto les ayudaría a las personas de mi cuadrilla si quiere esta tarde se lo pregunto que tenemos pintxo

hablar de la moción que traemos hoy sobre la mejora de la enseñanza de lengua y literatura castellana en nuestro sistema educativo sabemos que nos vamos a quedar solos lo sabemos y sabemos

soledad iluminadora alguno entenderá por qué digo eso pero es esa soledad que uno se siente confortado porque siente que está haciendo verdaderamente lo que tiene que hacer y porque siente que hay un gran número de ciudadanos que le acompaña vamos a ver primero voy a ir repasando un poquito

la verdad es que nuestro grupo en estos temas a veces se siente como casandra todo el rato hablando de cosas malas hablando de malos datos previendo resultados

mucho caso vamos a ver recuerdo

sacan en las pruebas de acceso a la universidad quince puntos menos que la media española en lengua

eso es así y el porcentaje de aprobados es del setenta y seis coma veinticinco cuando la media en toda españa

yo creo que ese es un dato que no podemos negar es un mal dato pero

mal mesedez isiltasuna es sobre todo marca una tendencia muy negativa porque evaluación

son peores es decir está ahondando en una tendencia negativa quiero recordar también

el cuatro por ciento y tenemos el grupo de alumnos excelentes más bajo el cuatro por ciento quiero recordar también que estamos a la cola según los informes pirls de dos mil dieciséis en comprensión lectora y estos son los datos que yo llamo casándricos que repetimos y repetimos y repetimos

remarcamos que la tendencia es negativa y no vemos que se pongan resultados la evaluación que tenemos diagnóstica propia

nos vuelven a decir que tenemos los peores resultados

no solo en lengua y literatura castellana sino también en euskera en

no queremos hablar siempre de cosas malas por eso a menudo traemos aquí la fp como un éxito un éxito de la consejería de educación

porque es una ley que va a pasar a la historia como una gran ley pero claro lo demás es que hay que decirlo hay que decirlo

les pedimos que hagan un plan porque ustedes nos van a sacar ahora

y lo que vemos es que prácticamente son todos repetidos con pequeños cambios pequeños añadidos pequeñas cosas

que fallan en lo fundamental que es resultados necesitamos queremos resultados estamos gastando

por alumno en la enseñanza pública estamos haciendo planes y planecitos y

es prácticamente la misma literatura con pequeños cambios y lo que demandamos que son resultados no los conseguimos

a ver cuál creo yo o cuál cree nuestro grupo que es la razón vamos a ver tenemos un currículum vasco y es un currículum vasco

la promoción la enseñanza la inmersión en euskera y claro esos esfuerzos quitan para abrirnos a otros campos y digo yo y eso por qué es así porque claro yo todavía recuerdo cuando aquí me decían porque si quieren que se acabe el euskera díganlo díganlo y yo miraba dentro de mí y decía nuestro grupo no quiere que se acabe el euskera

pues miren que a igualdad de amor de euskera hay quienes lo consideran una prioridad y

un aspecto a preservar más que es nuestro caso

un problema de nacionalismo el nacionalismo necesita ser diferente y por qué somos diferentes porque tenemos una lengua distinta

se habla en el dieciocho coma cinco de los hogares y eso hay que potenciarlo

esa diferencia que puede hacernos sentir distintos que puede hacernos sentir hasta mejores y mientras tengamos ya les he dicho que iba a blasfemar un poco

vamos a tener resultados muy pobres en otros

hablamos siempre de que queremos formar en competencias queremos enseñar a aprender

crear una masa crítica pues miren

la capacidad crítica de los estudiantes se adquiere con la cultura con cultura y la cultura fundamentalmente es una capacidad de comunicar lingüística y literariamente

no solamente por los textos porque hoy en día la comunicación aunque digamos que es literaria tiene otros soportes

la batalla de las termópilas sin ver sin ver la película de los trescientos pero

la cultura fundamentalmente basado en la literatura da valores da puntos de vista y construye la capacidad crítica por eso es fundamental por eso es fundamental sin una buena capacidad de comunicación sin una buena capacidad

de lenguaje sin una buena capacidad de adquisición de

no podremos tener jóvenes críticos tendremos jóvenes que se creerán la wikipedia

pero vamos que hay que aplicar un poco el sentido crítico a todo digo yo y por eso nos parece insoportable como a

a nosotros nos parece insoportable estos resultados en lengua y literatura castellana primero nos aíslan de quinientos

de quinientos millónes de castellanos parlantes segundo empobrece la capacidad crítica

tercero nos dejan comparativamente en una situación pues francamente que no es para levantar la cabeza un poco vergonzante

y el problema es que esto va a peor a peor cada evolución es a peor

pero reflexionando sobre cuál es la causa la causa es haber hecho del euskera

no un aspecto fundamental más a defender sino la piedra angular la piedra angular de todo el sistema educativo

importancia comparativa y no es un problema de ustedes quieren el euskera o no porque mire tanto como yo el que quiera pero más que yo nadie es un problema de utilizar el euskera de una forma

como herramienta de distinción somos distintos hasta podríamos decir somos mejores no somos como otros tenemos en nuestra derecho a nuestra diferencia y a nuestro trato diferenciado

hablan en euskera las sociedades mayoritariamente nacionalistas y esta lo es

por lo que estadísticamente es menor es decir aquí

nuestro idioma y nos definimos por aquel que estadísticamente es hablado por menos personas es una característica que a mí siempre me ha llamado la atención miren señores somos iguales que todos tenemos nuestros propios tesoros

pero no los podemos convertir en tótems ni

convertirlo en un tabú lo que tenemos que hacer es aumentar la capacidad comunicativa

con el mundo con el mundo y fomentar la comunicación literaria

a libros porque hoy la comunicación literaria tiene muchos soportes para que seamos capaces que una vez que los jóvenes hayan aprendido a aprender tengan la capacidad de tener un sentido crítico sobre lo que han aprendido muchas gracias

bi eremu hace unos meses a iniciativa del partido popular debatíamos en relación a la implicación progresiva y generalización de la educación trilingüe en el sistema educativo poco después debatimos de la política educativa del gobierno vasco en relación al inglés a iniciativa

que nos están mostrando su opinión sobre el tratamiento de las lenguas en el sistema educativo no universitario y hoy debatimos concretamente de lengua castellana y literatura en la prueba de acceso a la universidad

desde elkarrekin podemos creemos que el tratamiento de las lenguas en el conjunto del sistema educativo vasco es un tema muy importante y que debemos de tratar debatir e intercambiar opiniones nunca está de más pero a veces

por el castellano y el inglés y para nosotras para elkarrekin podemos que tenemos claro que vivimos en un contexto plurilingüe con una segunda lengua oficial

es dar pasos creemos que tenemos suficientes datos objetivos ya para tomar medidas creemos que es el momento de poner sobre la mesa en el debate propuestas y alternativas de cambio y mejoras reales

que ya es hora de dejar de jugar a la sokatira con las lenguas y compartir propuestas al fin y al cabo las lenguas están para esto para entenderse para que nos entendamos proposamen horiek

genituzkeen estandarrak lortzen según la sexta encuesta socio lingüística del gobierno vasco

es enorme en el grupo de edad de dieciséis a veinticuatro años un cincuenta y cinco coma siete por ciento de vascohablante han aprendido el euskera fuera del entorno familiar y en numerosas ocasiones

presencia del euskera según las proyecciones en veinte años un noventa por ciento de la población menos de veinte años será vascohablante no obstante

con una óptima capacidad de comprensión del euskera pero con habilidades productivas limitadas integrados en contextos

actual este sector de la población tendrá escasas oportunidades de emplear el euskera fuera de la escuela hau da

desde heziberri se propone un sistema plurilingüe con el euskera como eje central marcándonos como objetivo los siguientes niveles de competencia

be uno del marco común europeo de referencia para las dos lenguas oficiales al finalizar la educación primaria y alcanzar el nivel

como ya hemos dicho de las evaluaciones realizadas se desprende que el nivel del euskera adquirido no siempre alcanza los estándares deseados por lo que es hora de debatir sobre los motivos reales

y a adoptar medidas y esto nos lleva a una realidad que desde elkarrekin podemos ya hemos planteado en todas las ocasiones que hemos debatido sobre lenguas y es que las investigaciones nos muestran que el actual sistema de modelos

ahora bien qué proponemos en nuestra opinión es necesario avanzar y caminar hacia un modelo lingüístico único y flexible y basado en el diagnóstico del centro educativo debemos de tener en cuenta que el punto de partida

son muy diferentes en cada centro apostamos por que sea la propia comunidad educativa quien elabore su proyecto lingüístico con el apoyo que necesite de la administración creemos en que una opción podría ser un modelo lingüístico trilingüe con el euskera como eje vertebrador

lengua quedaría a elección del propio centro para ello previamente sería necesario consensuar un marco general común que todas y todos respetemos el otro gran reto que tenemos conseguir un acuerdo entre todas las fuerzas políticas

duen proposamen bat en este sentido hemos presentado una enmienda a la totalidad en la que instamos al departamento de educación a diseñar junto a la comunidad educativa y el departamento de cultura euskera y deporte un plan estratégico para llevar a cabo las medidas necesarias

y caminar hacia el desarrollo de un modelo trilingüe a partir del proyecto educativo lingüístico de cada centro

y con el euskera como eje a poner las medidas necesarias de apoyo para que cada centro educativo diseñe su propio proyecto lingüístico

al final de cada etapa obligatoria creemos

también mejoraran los resultados de la lengua castellana y literatura de las pruebas de acceso a la universidad mila esker eskerrik asko macazaga

bien buenos días hoy el partido popular nos trae una moción consecuencia de interpelación relativa a los resultados de la lengua castellana y literatura en la prueba de acceso a la universidad yo sí voy a intentar de introducir una cierta racionalidad

y creo que para jugar en el tablero debiéramos de estar todos en el centro del tablero sin necesidad de que para reforzar las ideas y los argumentos de uno necesariamente tenga que atacar al contrario

a los datos a los datos a los que hizo mención la señora bengoechea en su interpelación que son datos referidos a los resultados de las pruebas de acceso a la universidad

aunque se refiere solo a los datos obtenidos en lengua castellana y literatura los datos se pueden sacar de diversas fuentes

o que se analicen puede ser el estudio de la consejería gallega al que se hizo referencia en el pleno de control

las que se usen como fuentes nosotros nos hemos querido basar en estas últimas en las que ha realizado el ministerio de educación que son relativos al año dos mil diecisiete en la prueba de acceso a la universidad analizamos la prueba de acceso a la universidad que han realizado los estudiantes de bachillerato

ordinaria se podía analizar la convocatoria extraordinaria a la que se presenta el resto de alumnos o los que acceden a esta prueba mediante fp pero nos guiaremos por lo más genérico alumnos y alumnas procedentes de bachiller en convocatoria ordinaria

y porcentajes que llevarían a la confusión nos hemos centrado en la fase general de esta prueba

y de las que todos los estudiantes tienen como obligación evaluarse

puesto que en la fase específica el alumnado escoge materias

es cierto que en la materia de lengua castellana y literatura no sacamos la mejor media precisamente

el país vasco se sitúa en una media de seis coma tres ciertamente por debajo de la media general la comunidad autónoma que peor media saca en esta materia es baleares

le sigue en esa lista esto es significativo y evidentemente no nos situamos con ni tan siquiera un buen resultado entendiendo que solo una comunidad autónoma se sitúa por debajo de nosotros y que estamos por debajo de la media general nos siguen comunidades como valencia castilla y león andalucía la comunidad

y seguido inmediatamente por asturias pero además somos la comunidad autónoma que más presupuesto destina por alumno y desde luego debemos situarnos en los márgenes más altos esto es lo que nosotros pensamos como las dos últimas comunidades citadas es cierto

son las que peores medias sacan en materia de lengua castellana y literatura situándose por debajo de la media general y ahí está también cataluña y está galicia

no es el problema de la existencia de lenguas cooficiales como hemos podido comprobar en muchas ocasiones

ayuda a reforzar las demás asignaturas estamos en una comunidad integral donde tenemos un sistema educativo bilingüe además de estudiar una tercera lengua como es el inglés analizar solo una asignatura de la fase general

lo único que se hace es sesgar una realidad que entendemos que va mucho más allá es innegable

que analizamos y que se deberán tomar medidas para mejorar este resultado por ello en la enmienda presentado junto con el grupo nacionalista instamos al departamento de educación a que impulse la actualización idiomática y la formación en didáctica de las lenguas del profesorado de todas las lenguas del profesorado porque entendemos que hay que hacerlo así las dos son lenguas las dos son nuestras las dos son nuestro patrimonio y hay que darles tratamiento fundamentalmente en relación con el tratamiento integrado e integral de las lenguas promoviendo un plan de formación lingüística y de metodología del profesorado se insta además al departamento a que siga poniendo en marcha iniciativas y recursos de apoyo al alcance de la comunidad educativa para mejorar la competencia lectora del alumnado como una herramienta de comunicación básica y de fomentar su interés por la lectura de esto hemos hablado muchas también en la comisión de educación pero vayamos más allá

podemos ver que en idiomas tenemos buena media en general lo que se denomina como lengua cooficial la media es de seis coma cuarenta y seis y el país vasco se sitúa en una media del siete coma sesenta y seis

y nosotros alcanzamos una media de siete coma cuarenta y cuatro como vemos en ambas se supera la media y no precisamente por escasos puntos en historia la media es de un seis coma dieciséis mientras que la nuestra es verdad que ahí estamos mal

por eso nosotros defendemos y seguimos defendiendo que es posible y compatible y además bueno un sistema educativo plurilingüe en el que se estudia las lenguas cooficiales el euskera y el castellano

al inglés siempre hemos llevado como bandera el idioma del inglés en la educación pública vasca puesto que nos parece que es una competencia básica

esa competencia seguir mejorando los resultados en esta lengua sobre todo en un mundo globalizado en el que en algunos aspectos como la ciencia la verdadera lengua franca

de criticar el euskera o de criticar la utilización que entiende usted que algunos hacen del euskera o al revés es decir para defender el euskera tampoco hace falta minorizar

es que yo me niego a que dos lenguas que son mi patrimonio el de todos los ciudadanos vascos tenga que ponerse en cuestión

de nuestro acerbo cultural de nuestro patrimonio de nuestra forma de ser vascos

en estos debates aunque no se quiera hacer intencionadamente que se genere la sensación de quien sale como usted a defender un tratamiento especifico para la lengua castellana
critique al euskera y que la señora ubera se vea obligada a salir a tribuna ubera andrea zure txanda izango

amenazada por lo que usted dice porque creo que no es necesario ni hace falta llegar a esos extremos creo que la mejora de las unidades didácticas lingüísticas

como a la enseñanza del inglés de forma integral ese es el espíritu de lo que ha querido recoger la enmienda que planteamos con el grupo

las dos tenemos que sentirlas como nuestras y creo que determinadas expresiones no ayudan precisamente a crear

donde estime conveniente y esa es otra cuestión distinta a la que hoy estamos planteando aquí o debiera de serlo por lo

tenemos que mejorar en lengua castellana y literatura sabe bien que en nuestro grupo nunca nos oponemos a avanzar en todo aquello que tenga margen de mejora pero dentro

el documento denominado bases para el acuerdo elaborado a partir de las reflexiones de representantes de la comunidad educativa

dice así la escuela plurilingüe no es solo aquella que enseña varias lenguas

irakurri dituenak por tanto sistema plurilingüe con el euskera como eje tratamiento integral e integrado de las lenguas proyectos lingüísticos de centro metodología y formación en didáctica de lenguas importancia en la competencia lectora esos

vamos a ver yo no entiendo cómo con tantos planes que tenemos con tantas buenas ideas que tenemos

y cada vez estamos peor es que yo pediría un poquito más de sentido crítico porque lo cierto es que

y a la hora de la verdad los resultados son peores hay dos cosas que yo desde luego se repiten totalmente y no creo que sean ciertas

es un idioma minorizado vamos a ver el euskera en la sociedad desde luego es un idioma minorizado pero en la educación no es un idioma minorizado al contrario el idioma minorizado en la educación es el castellano

cuánto se da el euskera es un idioma minorizado en la sociedad pero no es minorizado en la educación eso para empezar otra

a mí me parece que es incorrecta no no porque el castellano está garantizado

no está garantizado puede estar garantizado como algo pues eso un uso muy básico muy

pero en toda su capacidad no está garantizado tampoco lo está el euskera tenemos un problema gordo me decía la señora ubera que yo solo venía a hablar de la lengua y la literatura castellana en este contexto es cierto pero en la moción el otro día

en la interpelación a la consejera hablé también mucho

en euskera vamos a ver o sea que esas cosas yo no creo que sean verdad se me preguntaba que

este tema aquí lo hemos dicho creemos que el conocimiento verdaderamente en toda su potencialidad

y en este caso estamos hablando de la lengua y literatura castellana es lo que permite crear ciudadanos críticos ciudadanos críticos queremos por una parte ciudadanos que puedan

y por otra parte además pedimos que todo ese aprendizaje pase por un tamiz crítico bueno

el tener el idioma que sea y ahora estamos hablando del castellano en un nivel de sofisticación y de profundización en su utilización óptimo porque

pero lo que nos hace pensar lo que nos hace pensar es el dominio de una lengua

a ver señor pastor usted ha oído eso de

está en las escrituras usted habla que hay que situarse en el centro en el centro mire le voy a decir una cosa el centro por sí mismo es estéril el centro por sí mismo

compartiendo el cuadrilátero lo que hace al centro fértil

de poner ideas opuestas en juego para alcanzar mediante el acuerdo ese centro entonces el centro es fértil

que no sea ni fría ni caliente y que venga aquí y que diga

lo políticamente correcto para quedar por encima del bien y del mal porque además creo que esa es una postura que los ciudadanos

yo quiero estar en el centro pero quiero llegar a él no quiero surgir en el

el centro fértil es el que se alcanza contraponiendo ideas fuertes opuestas y debatiendo
sin ningún prejuicio muchas gracias eskerrik asko de bengoechea anderea

nosotros como ya hemos mencionado en mi anterior intervención nos mostramos cooperativos para sentarnos

un acuerdo de mínimos que nos permita superar el marco actual por lo que nos vamos a abstener en la votación de las enmiendas de los grupos partido nacionalista vasco partido

ya que no compartiendo la totalidad de sus enmiendas

y mostrar así nuestra disposición a ello mila esker eskerrik asko macazaga anderea

andrea euskal sozialistak pastor jauna bertatik sí desde el escaño rápidamente simplemente para hacer una precisión

bengoechea yo no pienso que el centro sea estéril ni yo me considero que esté jugando a hacer de centro no pero me parece que en un tema tan sensible tan delicado y tan importante como el tema de las lenguas

los idiomas como arma arrojadiza de uno contra otro porque eso hace imposible llegar a acuerdos y creo que hay una base común importante

de encuentro y eso no significa ni que uno haga dejación de sus posiciones ni que se deje engañar por el contrario sino que haya disposición voluntad y disposición de encontrar un territorio común que necesariamente vamos a tener que hacerlo porque si nos dedicamos a tirarnos el idioma a la cabeza

y sea útil para los ciudadanos por lo tanto en ese espíritu que entiendo que debe presidir y que presupongo que a todos anima yo les animo a que apoyen ustedes la enmienda que hemos presentado con el partido nacionalista vasco

nota media de la materia en el estado español seis coma dieciséis en euskadi la media es de seis coma cincuenta y tres

historia de españa que en españa lengua extranjera inglés

por tanto los alumnos y alumnas vascas saben mucho más inglés

alde guztietan sobre el centro

centro fértil yo no considero que el centro sea estéril si

y dice que el centro fértil es cuando ideas opuestas se ponen en juego para llegar a acuerdos y entonces llego a la conclusión de que en estos momentos existe ese centro fértil en euskadi en eso es en lo que están trabajando decenas de personas tratando de llegar a unos consensos mínimos sobre unas bases

dice así el euskera es la lengua propia de euskadi no es la única pero solo nosotros la poseemos el euskera convive con la otra lengua que también es de euskadi el castellano las lenguas no son excluyentes sino prueba de la diversidad pluralidad e integración compartimos la necesidad de mejorar esa convivencia con el objetivo de que sea más igualitaria

de mayor cohesión social eso dice el programa de este gobierno vasco hortaz gogoeta hau konpartituz gero neurtu ditzagun hitzak

egun on legebiltzarkideok durante los últimos años la precarización de la vida de la gente ha sido una constante

como saben todas y todos ustedes y de manera especial la precarización de las condiciones laborales las cifras de precariedad laboral en euskadi suben de manera preocupante mes tras mes trimestre tras trimestre

y la calidad en el empleo es por ello ya una de las principales preocupaciones de la ciudadanía según diferentes encuestas y estudios de opinión

especialmente las dos últimas del partido popular y del partido socialista han arrasado de tal modo con el estatuto de los trabajadores que han impuesto lo que ellos llaman

de los derechos laborales ha sido tan intenso este proceso que el empeoramiento de las condiciones en que cientos de miles de trabajadoras y trabajadores desempeñan su trabajo hoy

hoy en el año dos mil dieciocho las condiciones de trabajo son peores que las de hace treinta años

de jóvenes que viven condiciones de vida y trabajos peores que las de sus padres y sus madres y en muchísimos casos peores incluso que las de sus abuelos y sus abuelas

está completamente inmersa en él las cifras no dejan lugar a dudas en nuestra opinión en euskadi en dos mil diecisiete

temporal esta cifra sube y sube cada año si no recuerdo mal tres puntos en dos mil diecisiete respecto a dos mil dieciséis en euskadi el noventa y tres por ciento de los nuevos contratos son temporales

no llegan a un mes de duración el noventa y cinco por ciento de los contratos a tiempo parcial son también temporales hoy en el oasis vasco la precariedad laboral

nosotros pensamos que a la luz de estas cifras el gobierno

deberían ser bastante menos triunfalistas hablando de las cifras de desempleo hablar de paro técnico en esas circunstancias es un insulto a la situación de precariedad

especialmente entre los jóvenes hoy en el oasis vasco el ochenta y tres por ciento de los jóvenes están con empleo precario el ochenta y tres por ciento

son datos de los informes del consejo de relaciones laborales de euskadi pero sobre todo es la cruda realidad que cuenta cualquier joven y cualquier trabajador con el que se hable pero eso sí para ello hay que hablar con los jóvenes y con las y los trabajadores y difícilmente se puede hablar

elementos como la mesa de diálogo social llegando a pactos unilaterales con confebask y es que la tan cacareada recuperación económica de la que tanto presumen algunos en este parlamento

pero esta precariedad laboral además tiene un claro sesgo de género la precariedad

y mujeres hace que las mujeres vascas tengan más dificultades para salir adelante más dificultades para ser autónomas más dificultades para ejercer en igualdad de condiciones sus derechos para muestra un botón las mujeres vascas

sin contrato también cuando el consejo de relaciones laborales estuvo en este parlamento se demostró que la mayor precarización está en las mujeres

tiene que ser abordada y combatida en nuestra opinión también porque es una realidad impuesta mediante decisiones políticas con fines claros aprovechar la crisis económica para instaurar un modelo productivo y un mercado de trabajo en que los beneficios empresariales se mantengan y aumenten en base a una mayor explotación de las

antes en una intervención la señora de bengoechea y decía que a nadie nos gusta decir que esto se hace pero esa es la realidad ese es el nuevo modelo

pretenden que se instale definitivamente y de manera irreversible

de la gente la sucesión de reformas laborales emprendidas

y del partido socialista han dado por lo tanto como resultado un modelo laboral cuya característica principal es la precariedad estas reformas laborales han dado como resultado que más del noventa por ciento del empleo que se genera sea precario temporal sin derechos

ejemplo claro de las nuevas formas de explotación en las que al trabajador se le obliga a situarse fuera del paraguas devaluado del estatuto de los trabajadores o de los convenios colectivos

de los derechos económicos y de los derechos sociales y como consecuencia se disparan también los niveles de desigualdad reformas que han degradado las condiciones de trabajo y de vida de la clase trabajadora y han desequilibrado las relaciones laborales a favor de la patronal una patronal por cierto

representantes quienes nos recomendaban hace no tanto trabajar más y ganar menos resultaron ser además de unos explotadores unos chorizos en toda regla

entre ellos nada más y nada menos que quien fuera presidente de la patronal estatal coe de la que forma parte de manera absolutamente voluntaria la patronal vasca confebask una patronal vasca que está muy cómoda con esta situación y frente a esta realidad

y reventar la mesa de diálogo qué hace el gobierno vasco esa es una pregunta que se hacen seguramente decenas de miles de trabajadoras y trabajadores precarios de este país nosotros pensamos que desde luego asumir objetivos claros cuantificables y evaluables en la reducción de esta precariedad no nosotros pensamos que eso no se está haciendo hasta este momento porque si bien es cierto que el gobierno hace bandera de algún compromiso como bajar la tasa del paro por debajo del diez por ciento no dice nada sobre qué objetivos quiere alcanzar en cuanto a las cuestiones de precariedad

y ese es precisamente el objetivo de nuestra iniciativa de hoy que asuma objetivos concretos y cuantificables en relación con la precariedad laboral y las condiciones

objetivos concretos nosotros sabemos que esto no es tan fácil como hablar de reducir el paro al diez por ciento

con los vientos de cola de la recuperación macroeconómica y en una situación de devaluación de las condiciones laborales es casi como no decir nada porque nosotros pensamos que muy mal se tendrían que hacer las cosas para que al acabar la legislatura

con este gobierno y con cualquiera y lo hemos dicho en alguna ocasión si donde antes había un trabajo más o menos digno ahora hay dos precarios la tasa de desempleo se reduce pero a costa de precarizar el mismo no necesariamente tampoco por la creación de nuevo empleo por eso el gobierno lleva toda la legislatura repitiendo ese objetivo relacionado con el paro

y que podrá venderlo como un objetivo cumplido sin hacer gran cosa y el otro le exige tomar medidas

confrontar con una patronal con un confebask con el que está a partir un piñón por eso nosotros

que le tocaba hacer determinados deberes los que en nuestra opinión lleva casi dos años sin hacer con el acuerdo en torno a la iniciativa de hoy pensamos que pnv y partido socialista de euskadi no van a recuperar

en precariedad laboral pero pensamos que sí pueden cambiar la actitud y sobre todo la actitud del gobierno y demostrar que por lo menos tiene voluntad de preparar el examen de estudiar y hacer los deberes

es una deuda una deuda con una clase trabajadora que está en condiciones cada vez más insoportables

en sus derechos y condiciones de vida y este gobierno tiene que pasar en nuestra opinión de las palabras a los hechos tiene que pasar de objetivos retóricos

evaluables en relación con la precariedad laboral por eso desde nuestro grupo pensamos que cuando el gobierno vasco plantea políticas de empleo

lo hace más allá de los epígrafes sino que la calidad en el mismo debe ser una prioridad absoluta

y concretas en relación con la precariedad laboral objetivos que vayan más allá de expresar una genérica necesidad de crear empleos de calidad

creemos que el gobierno tiene que decir en qué punto concreto en qué nivel pretende que se sitúen algunas de las variables que he mencionado y otras muchas que no he mencionado ese era el objetivo de nuestra iniciativa creemos que en el punto dos de la misma se recogen unos deberes determinados al gobierno vasco porque pensamos

haciendo esos deberes pensamos que tenemos que tener o que el gobierno tiene que tener objetivos

a los problemas de precariedad laboral que son muy graves en este momento

y por eso traíamos esta iniciativa y esperamos que una vez aprobada el gobierno haga caso de la misma digo esto porque recientemente

una proposición no de ley con los votos de los grupos de la oposición y con el voto en contra de los grupos que apoyan al gobierno y a mí se me ocurrió decir que como se aprobaba una proposición no de ley el gobierno tendría que cumplir y enseguida algún miembro de los partidos que apoyan al gobierno

no son de obligado cumplimiento para el gobierno yo pienso que un gobierno que no cumpla proposiciones no de ley más allá de la obligación legal o no es un gobierno que devalúa también el elemento democrático de esta cámara representativa pero hoy la iniciativa va a ser apoyada

y entiendo que eso debería ser al menos un elemento de garantía para que el gobierno recoja y plantee esos objetivos concretos y cuantificables eskerrik asko

de noviembre de dos mil diecisiete señor hernández congreso de los diputados

por el grupo socialista sobre precariedad laboral el objetivo poner fin a la precariedad laboral el exceso de temporalidad la alta rotación o el trabajo a tiempo parcial no deseado método para ello reforzar la negociación colectiva como fuente del derecho instrumento que se propone capacidad normativa que reside en el congreso de los diputados

modificación del estatuto de los trabajadores ese paraguas que usted dice que le corresponde al parlamento en este caso el estatal dar ese paraguas a los trabajadores el estatuto de los trabajadores el de los convenios colectivos

le corresponde a la concertación social entre patronal y sindicatos que son sus protagonistas seis días después de su presentación se somete a

de aquella votación es que se aprueba aquello con lo votos a favor del partido socialista de unidos podemos y del partido nacionalista vasco

a acuerdo aquí en este parlamento por algo será algo compartiremos y el origen y yo se lo he reconocido muchas veces que la reforma laboral

no deberían ya de continuar fueron momentos también diferentes

quién destruyo determinadas base fundamentales en la protección de los derechos de los trabajadores por tanto el pasado es el que está y el presente es el que nos tenemos que poner porque está bien que me diga usted esto de hacer los deberes pendientes pero a ver si ustedes son capaces alguna vez también de traer el temario concreto porque

ha introducido en la transaccional y inicio así mi intervención porque hoy debato en esta cámara con usted y con el resto de parlamentarios

de febrero vale y que coincide en este objetivo que los socialistas ya hemos llevado en anteriores ocasiones al congreso de los diputados verdad y porque estamos interesados y porque nos ocupa y nos preocupa

lo del tema de la precariedad por tanto compartimos con el proponente no lo puede obviar la preocupación por esta precarización del mercado de trabajo y coincidimos también con ustedes

ha tenido consecuencias nefastas y ha afectado directamente a la calidad del empleo al nivel de los salarios y al núcleo básico de la negociación colectiva hasta ahí no tenemos ninguna dificultad de entendimientos sabemos reconocer cuál es la situación la creación de empleo que ofrece algunas estadísticas excepto las que utiliza la señora bengoechea que deben de tener un origen del partido popular

de la temporalidad y de la parcialidad eso no queda ninguna duda cada vez hay más contratos temporales muchos de ellos de muy corta duración lo que genera inestabilidad mayor inseguridad laboral y menor productividad y cada vez más de esos contratos además lo son a tiempo parcial y en muchos casos esta parcialidad es involuntaria según los datos del dos mil diecisiete en euskadi para reducir en ocho mil seiscientos veintiséis personas la tasa de desempleo se realizaron un total de novecientos cincuenta y ocho mil cien contratos

fueron indefinidos el resto era contratación temporal y es verdad el cuarenta por ciento usted lo ha mencionado eran además a tiempo parcial esta forma de contratar se ha convertido en un elemento de precarización y explotación laboral que no tiene parangón con fechas con situaciones igual anteriores verdad precariedad en la que además hay que tener en cuenta que afecta fundamentalmente a colectivos más vulnerables hablábamos de los jóvenes y hablábamos también y hay que mencionarlo de las ahora bien hasta aquí lo que puedo compartir con usted porque el gobierno vasco no es cierto que no haya asumido compromisos concretos a este respecto en el acuerdo para construir una euskadi con más y mejor empleo más equilibrio social más convivencia y más y mejor autogobierno

para la acción del gobierno de coalición recoge un compromiso claro que es el empleo de calidad y este es un concepto que viene intencionadamente unido ligado porque el objetivo no es reducir la tasa de desempleo

por eso la apuesta es por el empleo de calidad no por cualquier tipo de empleo

a este objetivo en lo que incide el programa marco por el empleo y la reactivación económica dos mil diecisiete dos mil veinte del que le recomiendo no solo la lectura del resumen ejecutivo

de su concreción y sobre todo de sus indicadores de evaluación y objetivos a conseguir porque los tiene

cuando recoge además en este documento que es un objetivo general del programa favorecer un mercado de trabajo que ofrezca un empleo de mayor calidad que se refleje claro las cosas hay que ponerlas hay que concretarlas en una menor temporalidad en una menor parcialidad o por lo menos una parcialidad no deseada en una profundización en el avance en materias de seguridad y salud laboral

en los recursos humanos pero voy a ir más allá de la discrepancia porque yo creo que ustedes y nosotros y el grupo nacionalista hemos sido capaces de ir más allá verdad de lo que nos desune y nos hemos sido capaces de centrar en lo que nos une o en lo que compartimos

el mismo acuerdo entre las mismas fuerzas aquí que en el congreso de los diputados los tres grupos consideramos importante que este parlamento muestre hoy su compromiso por el avance

y firme para que en el ámbito de sus competencias trabaje en la reversión de este proceso y de ahí el compromiso de la cámara en utilizar su capacidad legislativa la capacidad legislativa que tenemos dentro de las competencias que asisten a esta cámara para contribuir a ese objetivo de disminución real y efectiva de las tasas de precariedad a través de las leyes que podamos aprobar

y de forma multidisciplinar una tarea que ocupa y que bajo nuestro punto de vista debe seguir ocupando también al gobierno vasco

empleo de calidad empleo seguro la reconoce como un objetivo clave en el que avanzar en esta legislatura es en este contexto de apuesta por el empleo de calidad donde los socialistas

entre otras la promoción de la negociación colectiva la lucha contra el fraude laboral la generación de entornos de trabajos saludables y seguros o la apuesta por las empresas socialmente responsables y para ello

controlar la contratación que se realiza supervisar el cien por ciento de los contratos a tiempo parcial incrementar la actuación de la inspección de trabajo

fomentar el conocimiento sobre la prevención y sus efectos beneficiosos en el incremento de la productividad de las empresas difundir los resultados de las campañas de inspección o el buzón puesto en marcha contra el fraude laboral

van a contribuir a conseguir un empleo de más calidad son

y deme otras en esta dirección va a estar siempre el empeño del grupo socialista y de los consejeros socialistas en el gobierno y también del gobierno de coalición

de la mayoría cuando llegamos a acuerdos en esta cámara

congratularme de lo que nos une y dejar a un lado lo que nos separa eskerrik asko eskerrik asko

la política de empleo adquiere por tanto gran relevancia ya que es un instrumento esencial para alcanzar un crecimiento económico sostenible y conseguir la necesaria cohesión social es por ello preciso formular la política de empleo en el marco de una estrategia integral que sirva de referencia para el conjunto de la sociedad estrategia integral

en este necesario marco estratégico es en el que se encuadra

en febrero de este año usted señor hernández registra una iniciativa con el título de precariedad laboral es decir nos plantea un debate sobre la calidad del empleo en nuestra comunidad y la calidad del empleo le adelanto para este gobierno es prioridad

como este me planteo inicialmente el análisis de su iniciativa

pequeños párrafos descriptivos uno las cifras que ni aporta ni menciona por otra parte y su preocupación en este caso compartida

en segundo lugar las modificaciones normativas reformas laborales ya se ha hablado también de esta cuestión por la señora castelo

estoy de acuerdo en tercer lugar el escenario de recuperación económica

y su extensión sin control en el oasis vasco añade hoy en esta tribuna no comparto la imagen que usted la imagen de

la conclusión de su justificación y le cito el gobierno vasco ha asumido compromisos concretos en la reducción de la tasa de paro reducirla al menos al diez por ciento pero no

y es por eso que usted formula esta proposición antes de centrarme

no comparto efectivamente el gobierno vasco ha asumido el compromiso concreto que usted menciona reducir las tasas de desempleo por debajo del diez por ciento a lo largo de la legislatura pero también ha comprometido o se ha comprometido con otros concretos objetivos algunos ejemplos

el bulto como dice usted estos señores escurren el bulto no

objetivos sobre internacionalización de pyme especialización inteligente

y por supuesto sobre la calidad del empleo que es transversal a todos los objetivos podríamos seguir la señora

volvamos a su iniciativa en la parte propositiva nos plantea tres puntos dos de ellos el primero y el tercero en los que nos mira a nosotros mismos al parlamento en el primero

de acuerdo en el tercero incluir como objetivo el empleo de calidad

legislativa de acuerdo y un segundo punto que usted que es el auténtico núcleo de su iniciativa que usted también lo ha indicado en su intervención

en él el parlamento vasco insta pone deberes

es decir cuantificar lo cualitativo y ello le cito en coherencia con lo reseñado en el

ocho del programa marco por el empleo y la reactivación económica

mis conclusiones en relación a su parte propositiva y en definitiva a toda su iniciativa primera usted considera y se desprende de su escrito que la estrategia que el horizonte de objetivos

es un referente adecuado y plantea una pequeña corrección en coherencia dice marca en rojo un pequeño detalle no dice al gobierno esta estrategia no se soporta

considera la estrategia como un referente adecuado segundo utilizando la misma argumentación también entiendo que considera el programa marco

y en tercer lugar estirando mi argumentación y atendiendo al ejemplo que utiliza

compromisos en lo cuantitativo hasta ahora tres buenas notas para el gobierno

no casan mucho su iniciativa a mi juicio con lo que nos traslada

y aquí sus deberes para el gobierno y aquí sus deberes al gobierno la corrección que usted plantea ustedes gobierno cuantifican peor de forma menos concreta y evaluable en relación con la calidad del empleo cuantifican peor lo cualitativo

esta cuarta conclusión mía sobre su iniciativa me llevo en febrero a volverme a estudiar la estrategia también el programa marco ya lo había hecho ya lo había hecho pero ahora lo hacía no desde aquella

sino desde su visión crítica y me ha sorprendido aún más la estrategia en positivo que la primera vez le estoy agradecido por ponerme a mí también estos deberes destacaría los antecedentes y el enfoque general la cuidada mejoría del trabajo la coherencia estratégica

tablas setenta y dos gráficos y tablas que ilustran y aclaran y dan múltiples versiones o visiones sobre cada punto de análisis el acertado resumen diagnóstico y por supuesto y desprendiéndome

diagnóstico los retos a abordar que efectivamente se están abordando para mejorar el empleo en euskadi activación cualificación y competencia generación de oportunidades igualdad de oportunidades sistema de empleo eficaz y eficiente y cómo no

con sus directrices de actuación se lo ha recordado la señora castelo

gestión avanzada de personas responsabilidad social y empresarial como contribución

contribución activa y voluntaria más allá del cumplimiento de las obligaciones legales

y en ese estudio personal he podido comprobar la profundidad de los objetivos y metas concretas y evaluables en relación con la calidad del empleo

solamente a los indicadores de actuación y de impacto del eje e

no hay que ir solo allí hay que mirar todos los indicadores

decía la señora castelo no solo el resumen ejecutivo hay que verlo todo porque es un error conceptual cuantificar lo cualitativo como si fuese cuantitativo es de diferente naturaleza

pero aun así me alegro de haber firmado este acuerdo que no quede por no incidir pero como ejemplo concreto de lo que le estoy diciendo recogerle una cuestión que traemos al acuerdo que

lo desarrollamos el avance en materia de seguridad y salud laboral fíjese lo que dice la estrategia

no aparece en los indicadores y la estrategia dice euskadi euskadi

una estrategia que cuenta con objetivos concretos a conseguir mediante el desarrollo de acciones organizadas en torno a unos ejes de actuación con una estructura

así como la evaluación de los resultados por esta razón esta directriz de la estrategia solo pretende recordar aquellos objetivos

es decir a efectos de recordar si leemos la estrategia

hace referencia a otras hay que leer la estrategia completa completa y con ese carácter cualitativo

otra cuestión que usted ha apuntado que lo veía ahora mismo lo ha apuntado en el debate una cuestión referida al tratamiento de género nota

desde la perspectiva de género también se analizarán desde la perspectiva de género

así hay que entender la estrategia y el programa marco en cualquier caso

mirarla que estudiarla la estrategia con estos nuevos ojos o mejor dicho con estas gafas amaitzen joan mesedez

consejeros señorías buenos días a todos señor hernández efectivamente comparto con usted

que la precariedad en el empleo es preocupante el hecho de que haya personas que quieran trabajar que tengan un puesto de trabajo y que con el salario que perciben no puedan hacer frente a las obligaciones que tienen pendientes

pues es una lacra para esta sociedad evidentemente en eso estamos todos de acuerdo con usted no creo que alguien lo quiera poner en duda que esas personas

pues es una situación que a toda la sociedad le preocupa y por eso precisamente la precariedad laboral es una de las grandes preocupaciones cuando nos hablan de lo que le quita el sueño a todos los ciudadanos y se sitúa entre si no es el primer puesto entre los primeros puestos de estas estadísticas efectivamente es cierto que esa precariedad laboral afecta encima a

y de trabajadoras más vulnerables afecta al empleo femenino afecta al empleo de los menores de veinticinco años al empleo denominado juvenil

muy baja o nula cualificación profesional pues entonces ya tenemos perfectamente la fotografía de cuáles son los trabajadores que tienen empleos precarios todo eso estamos de acuerdo todos los que hemos intervenido hasta hoy en este punto lo que no comparto es el análisis

de cómo está evolucionando esa situación desde mi punto de vista puede estar usted de acuerdo o no estar de acuerdo el mayor enemigo que tiene la precariedad

por sentido común cuando hay muchas personas buscando trabajo quien ofrece ese puesto de trabajo se puede permitir el lujo de hacerlo en unas condiciones pésimas e incluso porque siempre va a haber alguien necesitado que tenga que coger ese puesto de trabajo y suscribir ese contrato o incluso trabajar sin contrato porque la mayor precariedad para un trabajador es no tener

no no tenerlo en buenas condiciones sino no tener empleo por lo tanto entiendo que la creación de empleo y es en la situación en la que nos encontramos en estos momentos es positiva y va mitigando los efectos de la crisis que hemos tenido en dos mil once

de trabajo diarios el treinta por ciento de los empleos fijos se iban destruyendo año a año en esa época hasta

empezó a dar la vuelta la situación de creación de empleo y pasamos de destruir esos

a los datos del dos mil diecisiete la creación de mil setecientos puestos de trabajo

el quince por ciento de ellos fijos de los que se van creando nuevos hoy nos encontramos en una situación en la que el empleo fijo crece contrariamente a lo que ha dicho usted

y una de las mayores digamos situaciones de precariedad en la que se encuentran los trabajadores es que su empleo no sea fijo pues el empleo fijo está creciendo

tienen un empleo fijo el setenta y tres coma cuatro por ciento al cierre de dos mil diecisiete esa es la realidad esos son los datos del eurostat y los datos de la epa y los datos del instituto nacional de estadística

con claridad a mí me parecen buenos datos pero no me parecen buenos datos pensando

le digo que es un buen dato porque estamos cuatro o cinco puntos por encima de los trabajadores con contrato vigente fijo

es decir no solamente hemos recuperado el empleo fijo que se ha ido destruyendo desde dos mil siete hasta el dos mil trece sino que además estamos en cuanto

en dos mil seis es cierto que queda camino por recorrer pero por eso le decía yo que la evolución creo que no es correcta desde el punto de vista que usted nos ha

los trabajos fijos van mejorando insisto tres de cada cuatro empleos de hoy en día son fijos respecto del empleo juvenil de las tasas de los primeros momentos dos mil doce dos mil trece el empleo juvenil de los menores de veinticinco años ha caído en veinte puntos el porcentaje de parados

la mitad de los desempleados jóvenes menores de veinticinco años que estaban en paro en dos mil trece

su empleo creo que también es una buena noticia luego los jóvenes también tienen empleo luego veremos qué tipo de empleo tienen estoy de acuerdo con usted pero esa creación de empleo esa disminución

entre los jóvenes creo que son muy importantes el desempleo femenino

es uno de los colectivos más vulnerables pero tenemos que tener en cuenta que todo el empleo femenino que se destruyó durante la crisis económica se ha recuperado y hoy en abril de dos mil dieciocho hay en españa más mujeres trabajando

nunca y no estamos hablando de un crecimiento precisamente muy amplio por desgracia de la población afectada su situación de trabajar o no trabajar se han creado muchos empleos se ha recuperado el empleo femenino que se ha destruido y ese empleo es mejor es cierto que existe una brecha salarial importante y que tenemos que tomar y adoptar todas las medidas posibles para que desaparezca pero los datos

señor hernández estamos por debajo de la media de la brecha salarial europea que

y nosotros nos encontramos en el catorce coma nueve demasiado cierto pero estamos mejor que nuestros vecinos francia alemania

y lo que hay que hacer es seguir trabajando con los instrumentos que tenemos y que ya están puestos en marcha para hacer que sea menor si tenemos más empleo para todos esos colectivos vulnerables de los que hablaba al principio

pues el salario mínimo interprofesional está creciendo un ocho por ciento

un cuatro por ciento previsto para este año y una previsión de que sea el cinco y el diez por ciento para los dos años siguientes el diecinueve y el veinte con el objetivo de llegar a dos mil veinte con un salario mínimo interprofesional más alto y con veinte millónes trabajando ese crecimiento de empleo se está haciendo siete de cada diez de los empleos que se destruyeron durante la crisis se han recuperado ya y estamos creciendo anualmente

nuevos con lo cual podemos llegar perfectamente al dos mil veinte si seguimos aplicando las políticas que tenemos hasta ahora con millónes de personas trabajando y ahora nos centraremos en mejorar esas condiciones se ha subido considerablemente el salario mínimo interprofesional tenemos que

en la formación profesional los datos de españa los conoce y los del país vasco también y en esta tribuna se ha hablado en muchas ocasiones se crean más plazas porque

mucho más rápidos al finalizar los estudios y encima muy bien remunerados luego tratamos de corregir esa situación es por eso

su análisis pero sorpresivamente sí que voy a suscribir el acuerdo al que han llegado todos los grupos porque efectivamente lo que nos viene a decir es que las cosas

deben seguir haciéndose como se están haciendo podríamos añadir más cosas pero como comprenderá no puedo quedarme fuera de una votación cuando lo que se está diciendo en ese acuerdo es cierto y cuando lo que tenemos que hacer entre todos es unir el hombro para trabajar en mejorar las condiciones de todos los trabajadores y que estoy de acuerdo con usted que se pueden mejorar pero no vamos hacia atrás vamos

condiciones se van a mantener como están que no va a haber mejoras

y resignación tampoco conjuga bien con felicidad y la verdad es que las respuestas de este gobierno ante esta situación de precariedad no son para mostrarse muy optimistas el gobierno vasco no parece entender no toma conciencia no quiere reconocer la gravedad de la situación o defiende otros intereses aquí se ha hablado de la estrategia de empleo que ya nos presentó en su momento la señora artolazabal

y es que en esa estrategia no se habla con claridad de precariedad se mencionan como debilidades como riesgos se habla de que quizá uno de los riesgos puede ser que la creación de empleo no traiga consigo la calidad en el empleo y se habla de que es posible y que habría que evitar que a lo mejor puede pasar que no todas las personas tengan igualdad de oportunidades para acceder a un empleo digno pero es que eso una realidad nos presentan un plan te intenciones nuevamente de buenas intenciones

en nada por lo menos en nada que vaya a poder traducirse en lucha contra la precariedad

y yo también me he leído varias veces la estrategia y me la he leído en profundidad me he mostrado muy crítica y además nosotros hemos presentado una iniciativa en este sentido que ya nos permitirá discutir sobre ella

porque este gobierno cuenta con información prospectiva de mucho interés lo decía el señor aiartza que el propio documento recoge información gráficos

no se ha volcado en actuaciones concretas o en orientaciones concretas que debe tener ese plan eta hemen dago

pero este gobierno ha optado por dejar en manos de confebask las políticas de empleo de este país y lógicamente la lucha contra la precariedad laboral

de la patronal pero esto ya se lo preguntaremos también mañana al lehendakari la señora castelo también mencionaba el tema de la mesa de diálogo civil

pues nos explicará lo que está pasando en estos días pero el gobierno el gobierno no parece que comparta ese método del grupo socialista para luchar

hoy los grupos que sostienen el gobierno nos dirán que se preocupan de la precariedad laboral pero lo que está claro es que aunque se preocupen por esa precariedad laboral la precarización de la vida no ocupa a este gobierno prekarietate egoerak

podría haber sido un buen acuerdo de inicio de legislatura un acuerdo que nos pudiera haber permitido marcar la dirección de las políticas de empleo pero casi dos años después con una estrategia de empleo ya encima de la mesa y con las actuaciones de este gobierno pues un gobierno que da la espalda a esa mesa de diálogo civil

con una patronal que ni siquiera respeta los acuerdos que se toman en este parlamento pues nos parece que

la iniciativa es verdad que tiene una parte declarativa hay otra parte que nosotros pensamos que no es declarativa

finalmente a llegar a un acuerdo y a firmarlo hay una primera parte declarativa el primer punto que a mí me llama la atención que al señor

le parezca bien este punto porque luego en su discurso ha dicho todo lo contrario el primer punto que dice

es creciente y usted ha dicho aquí que no que como el partido popular ha hecho una serie de políticas en el conjunto del estado la precariedad es decreciente y vamos por el buen camino bueno

que sí es declarativo efectivamente lo deja claro la precariedad no es solo un problema real que tengamos ahora sino que es un problema real que va en aumento

he dicho que esa creciente precariedad

atmosféricas sino que responde a determinados intereses que son los que llevaron a hacer determinadas reformas laborales y sí miro al pasado

no como reproche sino que cuando uno hace un análisis de lo que está pasando tiene que hacerlo sabiendo que es lo que lo origina y esa es nuestra

de lo que lo origina la intención concreta de instaurar un nuevo modelo un nuevo modelo

de las empresas a costa de la degradación de las condiciones de trabajo un nuevo modelo que también comparto con algo que se ha dicho aquí que viene para quedarse

de la iniciativa donde está incluida la parte propositiva y esa era nuestro objetivo por eso presentábamos también una iniciativa de origen

era que los grupos que apoyan al gobierno y que cualquier otro grupo con ellos llegásemos a un acuerdo para decirle al gobierno

en relación con la precariedad no se ha marcado objetivos cuantificables y nosotros pensamos que eso es necesario y nosotros décimos

una serie de objetivos y por eso nosotros hacemos también en nuestra iniciativa mencionamos los planes del gobierno primero porque aunque nosotros hemos sido también críticos con ellos y los hemos criticado ya están pero es que en ellos se recogen una serie de epígrafes una serie de retos que sobre el texto sobre el papel que lo aguanta todo todo el mundo está de acuerdo y claro ustedes los han ido leyendo hoy aquí cuando me decían que sí que el gobierno tiene objetivos concretos

porque esos objetivos que ustedes marcan son epígrafes son frases que es difícil que alguien esté

menor temporalidad menor parcialidad impulsar la responsabilidad social de las empresas crear entornos de trabajo saludables claro muy bien pero cuánto vamos a medir eso hasta dónde queremos llegar eso es lo que nosotros le estamos diciendo

iniciativa y que se lo están diciendo ustedes porque la han firmado el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi que se ponga unos objetivos cuantificables concretos igual que ustedes han dicho que hay que bajar y que van a bajar la tasa del paro

algo que como ya les he dicho antes yo creo que lo hacen porque va a ser un arma de propagando muy fácil porque a eso se iba a llegar pero igual que han hecho eso

vamos a llegar a una temporalidad del equis por ciento vamos a llegar a un parcialidad del equis por ciento vamos a hacer que no haya

un montón de elementos que están relacionados con la precariedad en el trabajo que sí se miden en los indicadores

no se está marcando objetivos concretos cuantificables

que van mucho más allá de la temporalidad porque creo que el señor ruiz de arbulo ha dicho que el principal elemento para medir

es la temporalidad en el empleo creo que lo ha dicho usted si no recuerdo mal y yo no estoy de acuerdo no es el principal elemento es un elemento importantísimo pero incluso en empleos indefinidos hay gran precariedad y por lo tanto la precariedad no se puede medir con un solo elemento ni con dos

la precariedad se tiene que medir con viendo exactamente qué pasa en el mercado de trabajo

alguna iniciativa más y hemos interpelado también a la consejera de trabajo y justicia nosotros pensamos que el gobierno no estaba haciendo eso y nos alegramos de que hoy

lo que hoy vamos a aprobar en este parlamento porque creo que

el pleno del parlamento vasco muestra su preocupación por la creciente precariedad laboral y muestra su compromiso para trabajar en el ámbito de sus competencias para revertir el proceso de precarización laboral que estamos viviendo en los últimos años nos compete aquí al parlamento a trabajar en ello lo uno esto con el punto tres porque luego lo que quiero incidir en es el punto dos y el pleno del parlamento vasco se compromete a incluir como objetivo

legislativa y en el punto dos lo que aprobamos es que el pleno del parlamento le insta al gobierno vasco a mantener como referente de su actuación porque lo tiene la consecución de mercado laboral que ofrezca un trabajo de calidad

en la primera intervención desarrollando para ello programas sobre objetivos cuantitativos cuantitativos que se puedan cuantificar verdad

contratación temporal va más allá de la contratación a tiempo parcial va más allá de los salarios va más allá va más allá concrételo

se me elevan y no llegamos a lo que necesitan

le he intentado explicar en mi primer turno de intervención que desarrolla el gobierno vasco y en concreto el departamento de trabajo

le ha dado la visión en otros departamentos por tanto está muy bien que mostremos preocupación pero también está muy bien que tengamos estrategias coherentes como décimos

en esta iniciativa y es muchísimo más interesante todavía que además de mostrar preocupación influyamos en las políticas públicas que se desarrollan

no escurre el bulto cuando alguien se parapeta detrás del escaño

escurrir el bulto y yo creo que aquí hemos hecho los deberes tanto el parlamento como el gobierno porque con respecto a uno de los elementos importantes de precariedad laboral en este momento que tiene que ver

orden del día de esta mañana por parte de la portavoz del partido popular tenemos aquí lo que podemos hacer que es instar y solicitar a los agentes sociales protagonistas de esa necesaria revalorización de los salarios ese necesario incremento de los salarios les hemos instado desde este parlamento de forma unánime a que se produzca un alza

de los salarios de los trabajadores y eso también compete con otra cosa y este parlamento y este gobierno

el decreto de estructura para qué para dar un contenido y una prioridad a los convenios propios de la comunidad para dar mejor protección a los trabajadores ese es un instrumento que se ha puesto en marcha y que nosotros hemos instado muchas veces

y salir de las mesas de negociación no es la solución habrá que reconducir la situación sí

sí no ha sido acertada la decisión sí pero eso no impide a que esa mesa de diálogo social tenga que continuar con su labor y que la retirada de esa mesa diálogo social lo único que hace es perjudicar a aquellos

sindicatos y patronal para tener esa protección porque ahí también está la precarización hoy en día

en el tema de licenciado pero lo podríamos hablar también en otro lado porque hacer o decir que el smi ha subido a seiscientos treinta y cinco euros

pues en fin es lo que hay así que yo creo que lo que tenemos que hacer

eso no va a ser obstáculo para el partido socialista para intentar poner en este momento las medidas

revertir esa situación de precariedad laboral que tiene que ver con la contratación temporal con la parcialidad con los salarios con la seguridad y salud laboral y con la responsabilidad empresarial

muy brevemente la iniciativa no es mía la iniciativa es suya la iniciativa es suya usted con su iniciativa

miembro de esta cámara cuando registra una iniciativa marca el juego el terreno de juego del debate

es una iniciativa sencilla yo creo que no es una iniciativa sencilla es una iniciativa que tiene su complejidad eso sí es una iniciativa concreta es una iniciativa sobre una cuestión relativamente concreta

en cualquier caso la iniciativa es suya pero qué ocurre y me dirijo a usted

con el debate que salimos aquí atendiendo a una iniciativa concreta la que usted nos plantea

porque yo he querido atenerme a su marco de juego

pero lo que se hace es trampas en el debate sí

coge el teleobjetivo y nos acercamos o nos alejamos en función de lo que es lo que usted ha hecho o me entiendo que ha hecho también la señora

es decir de qué estamos debatiendo de empleo de calidad en el empleo o de herramientas para medir la calidad en el empleo

herramientas para medir la calidad en el empleo objetivos herramientas concretas

un marco más general para debatir con planteamientos más de principios

no tengo ningún problema para debatir de calidad en el empleo desde un

marco pero con sus límites con su terreno de juego tampoco tengo ningún problema que es lo que hemos hecho para debatir sobre objetivos sobre herramientas para medir que es lo que usted está pidiendo en la iniciativa

yo no entiendo que se hagan estas trampas decía

sí un plan de intenciones siempre hay intenciones en un plan siempre se va yendo de lo más amplio

o de lo más desde ese foco que decíamos antes a lo más concreto sí sí pero el debate de

versa de esos objetivos cuantitativos que usted dice de hecho ese concepto objetivos cuantitativos ha sido la clave del acuerdo estamos de acuerdo en eso pues entonces hablemos de eso no se nos escapen

yo veo objetivos cuantificables o que están cuantificados

no solamente el que dice usted por ejemplo apoyo al empleo juvenil

yo veo que está cuantificado otro crecimiento anual del cinco por ciento

está perfectamente cuantificado otro referido a la digitalización de las empresas modernización y digitalización de uno coma quinientos empresas yo veo que hay

no nos hagamos trampas no digamos que no hay esa cuantificación que a usted le parece adecuado y tal nosotros no tenemos ningún problema en avanzar porque por supuesto siempre hay margen de mejora sin ninguna duda no tenemos ningún problema pero

está está está cuantificado

se está midiendo y de esas mediciones se sacan de esos indicadores de esas mediciones se sacan conclusiones para seguir mejorando en esta cuestión

y por eso vamos a apoyar la iniciativa yo le he dicho que la temporalidad que desde luego no es el único índice que mide la precariedad

pero no es el único esa está mejorando y mucho mejor que en el dos mil seis pero también le digo

y que hay que subirlos y le puedo decir que el partido popular hace todo lo posible y de hecho si efectivamente tenemos presupuestos

que eso es competencia del gobierno y que el margen es que en tres años suban un ocho coma ocho eso es mejorar las cosas y desde el ministerio

los salarios de trabajadores efectivamente hay precariedad pero la estamos mejorando yo entiendo que ustedes nacieron en un momento tremendo con millónes de puestos de trabajo

en una situación de pobreza muy preocupante pero es que ese esquema esa fotografía

nacieron está modificándose gracias a políticas entre otros del partido popular las cosas son así señor hernández

hemos gobernado hemos hecho esto esta es la solución es lo que yo le digo

las recetas nuestras sí funcionan espero no poder nunca subir a la tribuna y decirle

de podemos han funcionado porque espero que no lleguen a gobernar nunca por el bien de todos los ciudadanos porque mire usted las políticas de izquierdas con el empleo no suelen funcionar bien ni por edad ni por conocimientos históricos le puedo dar los datos claros pero los buscaré y se los haré llegar un día

el número de trabajadores en españa de ninguna manera y estamos hablando de los años en los que accedían al mercado de trabajo los que nacimos en el baby boom los años ochenta

no los datos de afiliación a la seguridad social y de personas trabajando en españa cuando acabaron esos gobiernos del partido socialista eran los mismos que había dejado la ucd dato preocupante dice bueno igual era la coyuntura histórica pues curiosamente

y después llegan los gobiernos del partido socialista sabe en qué se incrementó el número de afiliaciones a la seguridad social en nada se destruyeron puestos de trabajo luego permítame señor hernández que le diga que yo no confío en las recetas

lo que nos suelen llevar a pesar de la ingente creación en esos dos períodos

porque esas recetas está demostrado que no sirven otras sí sirven y los datos están encima de la mesa que hay cosas que mejorar por supuesto que sí

el hecho de crear empleo no significa que ese empleo sea de calidad pero desde luego lo que no me negará

sigamos creando empleo como se está haciendo ahora apoyemos esas medidas y después mejoremos poco a poco como también se está haciendo la calidad de esos puestos
de trabajo muchas gracias eskerrik asko ruiz de arbulo jauna eta amaitzeko

mucho margen de mejora por decirlo de alguna manera mucho mucho y por eso nosotros hemos presentado una iniciativa en este sentido que discutiremos en los próximos días por lo tanto puede estar también tranquila la señora castelo porque esas propuestas las traeremos ese día las hemos compartido ya con ustedes en la iniciativa y tendremos oportunidad

en el plano teórico y después han bajado a lo concreto y nosotros y nosotras hacemos exactamente lo mismo ustedes

uno entre los resultados esperados uno que tenga que ver con la

y tal y como señala la ley de prevención de riesgos laborales es a ellos a quienes les corresponde velar por la implantación efectiva de las medidas preventivas más adecuadas en cada momento así como la vigilancia de la salud de los y las trabajadoras en sus centros de trabajo

señaladas es innegable que también los y las trabajadoras deben concienciarse de la necesidad del empleo de los equipos de protección

aquellas situaciones de riesgo evidente que puedan llegar a detectar en sus puestos de

haciendo cumplir las políticas de prevención de riesgos laborales y de empleo de calidad hiru hortaz eusko legebiltzarraren irizten du

a colaborar entre ellos para evitar accidentes de trabajo y lograr que la incidencia de las enfermedades laborales sea